en una semana en la que también fuera de euskadi se han sufrido casos de violencia contra las mujeres condenamos toda manifestación de violencia contra las mujeres o acto de discriminación sexual entendemos que la violencia sexista es la expresión más grave de las desigualdades entre mujeres y hombres

señora presidenta buenos días a todos y a todas y con brevedad puesto que el acuerdo está ahí todos ustedes lo han podido leer y lo que quiero

quienes han estimulado el acuerdo en la cámara a los representantes de la asociación

de trabajar conjuntamente el texto de este acuerdo y otras cuestiones que tienen que ver con importantes

en la intención de seguir participando y buscando esos acuerdos

a la economía social y a fórmulas desde luego características de nuestra forma

de generar empleo de generar economías positivas

y todos los grupos parlamentarios hemos presentado esta iniciativa sugerida e inspirada por personas ligadas al desarrollo de la economía al desarrollo del empleo al desarrollo de la economía social en el país vasco y desde luego personas que siguen profundizando como esta es la cuestión en fórmulas humanistas también en el ámbito económico empresarial este es el ejemplo

un recorrido que todos veremos se trata de dar forma experiencias empresariales que pueden ser factibles y que pivotan en torno a la persona a las personas a los trabajadores dentro de las empresas en la economía social ya funcionan

con valores humanistas cooperativas sociedades laborales en estas claves pero se puede seguir y se debe seguir y por eso entendemos

profundizando en el ámbito también de la empresa mercantil también de los modelos tradicionales de generación económica y producción

en el ámbito de la iniciativa que hoy presentamos las características principales serian una cultura de la cooperación la corresponsabilidad la preocupación por las personas ese es el principal elemento pero a eso hay que darle el contenido empresarial la participación de los trabajadores en la gestión

o en la propiedad o en todas esas cuestiones a la vez no de una o de otra manera serán cuestiones que se deban de

las fórmulas de participación de los trabajadores en las empresas no son nuevas

ligadas a la economía social han sido importantes reflexiones las que han hecho también asociaciones como

pero aquí vamos a darle una dimensión dentro del ámbito de la empresa tradicional dentro del ámbito de la empresa también mercantil o dentro de fórmulas que se vayan creando en relación con estas cuestiones también la prioridad de la sostenibilidad del proyecto colectivo sobre los

muy interesante estas fórmulas económicas también tener en cuenta las necesidades de la comunidad a las que se asienta esa responsabilidad social

dentro de la productividad dentro del crecimiento económico dentro del desarrollo económico tener en cuenta las necesidades de la comunidad en las que se asienta

fundamentales de esta iniciativa y desde luego vuelvo a decir que hay que agradecer a los promotores asociación de amigos de arizmendiarrieta su constancia

en relación con el acuerdo con un acuerdo como este también ha tenido que

pero entendemos porque el gobierno tiene que tener deberes en definitiva esta iniciativa esta proposición no de ley insta al gobierno vasco a elaborar a implementar un plan de actuación para la promoción del modelo inclusivo participativo vasco de empresa para su desarrollo además en la presente legislatura es una labor complicada yo entiendo que no sea una labor fácil hay que tocar muchos temas muchos ámbitos que tienen que ver con el desarrollo empresarial y desde luego

una tarea complicada pero dentro de esta legislatura tiene que completar en ese plan las siguientes políticas

característicos del modelo inclusivo participativo ampliándolo a la definición e implantación de las mejores prácticas en el establecimiento de políticas de comunicación interna

definición de objetivos selección de indicadores o sea elementos claves para el cambio propuesto también estimular igualmente la implantación de sistemas de participación de los trabajadores

de éxito que también tienen referencia en otros países de europa

habilitando vías de ayuda para realizar la aportación de cada trabajador identificar las mejores prácticas a nivel internacional en lo que se refiere a las políticas fiscales

otras instituciones esperemos que esta iniciativa también se pueda debatir y se pueda desarrollar en otras instituciones como son las juntas generales que tienen algo que decir en el desarrollo de este modelo inclusivo participativo de empresas no nos cabe ninguna duda hay que estudiar fórmulas jurídicas adecuadas

una cuestión como esta funcione crear un registro de empresas participadas colaborar en la

de la implantación del modelo inclusivo participativo colaborar en campañas de sensibilización dirigidas a empresarios y trabajadores para fomentar el modelo inclusivo participativo propuesto hemos de decir que además esta iniciativa

a los que nos hemos dirigido para preguntar su opinión y bueno lo han visto con buenos ojos como casi la totalidad o la generalidad del

sindical ha visto con buenos ojos también este tipo de fórmulas estos modelos bueno algunos

yo creo que también entronca bien eso que hemos dicho de fomentar el modelo inclusivo participativo con campañas dirigidas a empresarios y trabajadores

de algún reconocimiento eso está bien claro porque ahora tendremos que ver cómo funciona desarrollar actividades de formación

que afectan a la labor que el gobierno va a tener que hacer y también en una segunda parte esta iniciativa tiene una instancia al conjunto de las instituciones vascas a que de acuerdo con sus respectivas

en los resultados y capital de las empresas etcétera etcétera eso lo que decía antes también esta iniciativa será bueno que se debata

fiscales y yo creo que será bueno para completar este círculo de acuerdo el hecho de que en esos ámbitos y en esas instituciones se pueda ver esta iniciativa yo creo que bueno se ha dado un paso

en el acuerdo no solamente en el acuerdo de los grupos parlamentarios sino en el acuerdo también de los agentes económicos y sindicales y sociales

una andadura importante yo creo que lo bueno será también

ver algún ejemplo ver algún ejemplo de esta fórmula

despejado algunas dudas o facilitado las cuestiones jurídicas y el modelo

cómo puede trasladarse esta teoría interesante a la realidad y desde luego que no es nada

tiene que buscarse una cohabitación una colaboración entre el modelo mercantil tradicional los modelos de la economía social y este nuevo modelo que de alguna manera
debe tener un impulso muchas gracias presidenta eskerrik asko barrio jauna

muchas gracias presidenta hoy debatimos en este pleno

por la economía social que los socialistas habíamos considerado como uno de los ejes de esta legislatura

el equipo de la consejera maría jesús san josé y esta propuesta tiene dos características esenciales el modelo inclusivo el que parte de la convicción de que los trabajadores son un activo imprescindible para la eficacia y la competitividad

en el impulso de la iniciativa y el trabajo compartido que todos los grupos hemos llevado a cabo con un colectivo activo y comprometido con esta materia como son la asociación

saludo y que hoy nos acompañan en este pleno isiltasuna mesedez no partimos de cero venimos

que nos lleva que nos llevó el pasado cuatro de junio a celebrar un monográfico allí sobre la propuesta que nos planteó la consejera acordamos importantes

en el desarrollo de la economía social en euskadi y que están plenamente alineados con los ejes de actuación que nos derivan de las instituciones europeas pero que también afecta de una forma trasversal a otros planes de diferentes departamentos del gobierno vasco

el plan interinstitucional de emprendimiento de euskadi dos mil veinte la estrategia

el cuarto plan joven dos mil diecisiete dos mil veinte el plan universitario dos mil quince dos mil dieciocho

la economía social europea deriva de la estrategia europea dos mil veinte la cual sitúa como prioridades crear un valor basado en el crecimiento económico potenciar el papel de los ciudadanos en sociedades inclusivas así como crear una economía competitiva conectada y más respetuosa con el medio ambiente

desarrollo sostenible dentro de la agenda dos mil treinta donde se destacan los diecisiete objetivos mundiales de carácter trasversal

reto para futuro y que está liderando europa como es poner fin a la pobreza en el mundo así como proteger el planeta en aras a mejorar

dentro de estos diecisiete objetivos recogidos dentro de la misma la economía social se considera que contribuirá de forma sustancial y directa

innovación infraestructuras a la consecución de un trabajo

a la consagración de un modelo productivo y de consumo responsables a la consecución de objetivos de desarrollo sostenible y todo ello nos permitirá también avanzar hacia la igualdad de género dado que avanzar en economía social es también avanzar en igualdad

entre las diferentes resoluciones aprobadas en el indicado monográfico sobre economía social celebrado el cuatro de junio en este parlamento se aprobó una propuesta

de los grupos nacionalistas y socialistas vascos en la que se instaba a la dirección de economía social a elaborar

demás departamentos concernidos que permita la promoción de un modelo inclusivo participativo vasco de empresa en esta proposición no de ley el modelo inclusivo participativo de empresa

otra alternativa a tener en cuenta como un nuevo modelo de empresa tiene entre sus principios la primacía de las personas la creación de empleos de calidad

la adhesión voluntaria a dicho proyecto y el control democrático de sus miembros y permite la incorporación de los trabajadores a una gestión compartida a los resultados y a la propiedad de las empresas hemos tratado de este modelo en diferentes comisiones en diversas ocasiones a lo largo de la legislatura anterior y la actual y culmina hoy

conjunta y acuerdo unánime de todos los grupos para seguir avanzando en el desarrollo de ese nuevo modelo humanista de empresa en cuyo eje central ha de encontrarse como he indicado la igualdad de todas las personas que participan en ese proyecto empresarial buscando la promoción de empleos sostenibles de calidad favoreciendo la conciliación laboral

un incremento de la confianza a través de un modelo de transparencia informativa un mayor equilibrio de reparto de la riqueza en dicha que reduciría sin duda los conflictos existentes dentro de la misma todo ello dentro de un modelo vasco de empresa y en cuya promoción participarán

públicas vascas siendo muy importante realizar un trabajo en favor del desarrollo de la cultura necesaria para este cambio de modelo

sino que ese cambio de modelo también depende de los empresarios o directivos que han de iniciar el cambio y de los agentes y sindicales en este modelo se da prioridad a la sostenibilidad del proyecto colectivo sobre los intereses de cualquier grupo individual estrategias de crecimiento sostenible sobre estrategias de rentabilidad a corto plazo

en un porcentaje superior a la media del sector

actividades de responsabilidad social entre otras medidas dentro de la proposición de ley presentada de forma unánime con acuerdo de todos los grupos políticos de la cámara se insta al gobierno vasco

de un plan de actuación para la promoción de este modelo inclusivo participativo vasco de empresa que recoja los objetivos anteriormente indicados también

la creación de registros de empresas participadas a colaborar en la elaboración de modelos de evaluación

el modelo inclusivo participativo y se puedan ir evaluando posibles mejoras a colaborar en campañas de sensibilización que lo fomenten que son fundamentales y a desarrollar actividades de formación en gestión de empresas para trabajadores y sus representantes

para ello en el ámbito parlamentario se insta a la comisión

anual del cumplimiento de todas las recomendaciones recogidas en la proposición no de ley que hoy vamos a aprobar por unanimidad mi grupo parlamentario

que se va a aprobar en este pleno para fomentar el modelo inclusivo participativo vasco de empresa y creo que nos debemos de felicitar por el trabajo

y unánime todos los grupos de esta cámara hemos llevado a cabo en esta iniciativa desde el principio junto con la colaboración desde luego fundamental de la asociación de amigos de arizmendiarrieta sin la cual no hubiera sido posible y que creo que

con una proposición no de ley ese trabajo que va a ser importante para presentar ese nuevo modelo y ponerlo también encima de la mesa como una alternativa más para ser utilizada por todos nada más y muchas gracias

nuestra coalición en primer lugar lo que queríamos hoy es agradecer a la asociación de amigos

el trabajo que han hecho durante muchos años y que

la luz o un principio con la aprobación

el que hayan realizado este planteamiento que finalmente debatimos hoy en la cámara

con una implicación muy potente en nuestra realidad

agradecer que se haya contado con la participación de sindicalistas de solvencia demostrada en la defensa

de las y los trabajadores de este país para nosotros esta cuestión es muy importante y es una iniciativa cuyos objetivos nosotros

compartimos casi diría que plenamente sobre todo en base a cuatro elementos la consecución de una realidad de empleos de calidad en nuestro país

que no es una cuestión en absoluto menor la democracia económica y también el aporte de las empresas y de la realidad económica

en el que se desarrolla creemos que el modelo de

correctamente al menos desde nuestro punto de vista puede ser un modelo alternativo al modelo de empresa capitalista tradicional que tenemos en estos momentos y que presenta fundamentalmente las empresas de confebask

sobre todo en relación al papel de las y los trabajadores en las empresas un modelo alternativo en cuanto a la participación de las trabajadoras y los trabajadores en la gestión pero también en los resultados económicos de las empresas y un modelo alternativo en cuanto a la práctica cotidiana de las empresas

información y en la coparticipación en la toma de decisiones por eso nosotros pensamos que este modelo

que plantea tal vez una lógica diferente a la que estamos acostumbrados en nuestras empresas una lógica que contrapone la lógica del beneficio económico como único objetivo

a un modelo que pone de alguna manera el medio de vida de las personas que trabajan en las empresas como objetivo

a la lógica capitalista de funcionamiento empresarial porque proponer un cambio de modelo empresarial a otro más participativo en la propiedad y en la gestión para una redistribución efectiva

está dirigido fundamentalmente a privatizar beneficios y el control de la economía y las empresas y por el contrario este modelo plantea una posición nítida para la extensión de derechos de información y consultas sindicales en las empresas y establece mecanismos de control sindical que permiten ganar terreno a la parte trabajadora en la gestión

de las y los trabajadores en la economía del país y orientar la lógica económica en otra

no estamos hablando lógicamente del socialismo pero sí hablamos al menos de la implementación de una lógica económica que rompe en buena medida con la lógica hegemónica capitalista a través de objetivos y de prácticas alternativas en el mundo de la empresa por eso nosotros vamos a hacer especial hincapié en que no se debe confundir y no vamos a permitir

y confundir interesadamente la promoción de la extensión de un modelo empresarial como este que hunde sus raíces en el cooperativismo en el sindicalismo y sobre todo en las sociedades laborales confundirlo con el denominado nuevo modelo de relaciones laborales de adegi y confebask cuya intención es básicamente

y destruir la organización colectiva de las y los trabajadores es decir todo lo contrario de lo que se puede desarrollar con la iniciativa que se plantea hoy

después de ser aprobada o lo que sería peor que alguien tenga la tentación de dar la vuelta a la interpretación de los contenidos para considerar cualquier cosa como un modelo inclusivo participativo

nosotros estaremos vigilantes para que se pueda desarrollar en el sentido que les explico a la vez que creemos que se puede ir más allá para implementar la misma desarrollando iniciativas concretas para impulsar una verdadera democracia económica la lucha por la democracia económica es un eje troncal para nuestra coalición

de autogobierno ya planteábamos esta cuestión allí señalábamos que los países con mayor productividad son aquellos en los cuales los derechos de participación de las trabajadoras

sobre todo en relaciones con fusiones adquisiciones inversiones y desinversiones por eso planteábamos

tanto en el ámbito público como en el privado fortalezcan los procedimientos de información consulta y participación de las y los trabajadores

esta iniciativa proponíamos concretamente la inclusión en el capítulo del ámbito socio económico que los gobiernos de las diferentes instituciones vascas tuviesen obligación de promover junto a los diferentes agentes económicos y sociales el establecimiento de mecanismos de

así como la participación sindical y de las personas trabajadoras en la gestión y en la propiedad de las mismas nuestros planteamientos son por lo tanto compatibles con la iniciativa que tenemos hoy sobre la mesa pero tenemos claro no es compatible con los planteamientos y sobre todo con la práctica de la patronal de nuestro país por eso yo en cierta medida no comparto una de las afirmaciones que ha hecho el señor

si se desarrolla este modelo tendrá que convivir con el modelo que tenemos hoy en día con el modelo que representa confebask

con organizaciones empresariales que fomentan y realizan prácticas contrarias a las que se explican hoy en esta proposición no de ley el modelo de empresa inclusiva participativa

no puede ser lo que hace confebask en su día a día disfrazando de participación la vulneración sistemática de la negociación colectiva

y los trabajadores lo que asumimos hoy no es compatible en nuestra opinión con la práctica diaria en las empresas de confebask empezando por los derechos de información y consulta del artículo sesenta y cuatro información

y que en el día a día de las empresas de confebask es una batalla cotidiana de representantes de las y los trabajadores

y qué decir de la aplicación unilateral de condiciones de trabajo que se practica de manera cotidiana en las empresas de este país

te aplico un convenio que no te toca y si no estás de acuerdo ya si eso me denuncias

te aplico las cosas del convenio que a mí me interesan y lo mismo si no estás de acuerdo

podría pasarme toda la mañana poniendo ejemplos de cómo la práctica cotidiana de confebask es absolutamente incompatible con este modelo que discutimos hoy

en que el modelo que discutimos hoy sí es compatible con muchas de las aspiraciones y planteamientos de los representantes y las representantes de las y los trabajadores

es compatible como decía con los planteamientos que tiene nuestra coalición en cuanto avanzar a democracia económica

es que esta iniciativa no tendrá un buen futuro si a la hora de desarrollarla no se cuenta con los agentes

que me daba ayer un ya histórico sindicalista de este país que primero lo fue de lab y después de comisiones obreras y me decía es una buena iniciativa es un buen inicio es un buen poso pero depende mucho de cómo se desarrolle para que efectivamente podamos decir

otro tipo de modelo de empresas que podemos llamar inclusivos participativas o para que como tantas veces en la historia se pueda desvirtuar
una iniciativa que en nuestra opinión es loable es respaldable hemos firmado y vamos a votar eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

testuinguru orokor horretan jartzen bada puede existir como se ha dicho anteriormente diferentes tentaciones o diferentes lecturas erróneas sobre lo que hoy vamos a aprobar por poner un ejemplo y en referencia a la participación

perfectamente real y es un ejemplo que por cierto ya puse en la comisión cuando se dio la comparecencia de los

auto plagio pero es un ejemplo que refleja muy bien las carencias de hacer las cosas a medias imaginemos que un trabajador o trabajadora llevada de ese espíritu del capitalismo popular

mil euros posteriormente esta empresa que es una multinacional decide hacer un plan de restructuración a nivel global en el cual se contemplan cierre de plantas

esa empresa subirá su cotización en bolsa porque normalmente los inversores los mercados este tipo de medidas qué es lo que nos puede pasar con nuestro inversor o inversora trabajador trabajadora que quiere hacerse con una parte de la empresa

pero despedido y el directivo o directiva que toma la decisión de hacer esa restructuración cobrando un sustancioso bonus porque cobran en función del valor que le dan al accionista de la cotización de las acciones por tanto la participación

la participación no puede ser simbólica la participación tiene que ser real en la propiedad en la información en la gestión y en la toma de decisiones y eso es lo que este modelo fija con claridad y por eso entendemos que es un buen punto de partida

a los que queremos aspirar otra tentación que puede existir es la de contraponer este modelo colaborativo e inclusivo con la confrontación o la dinámica de confrontación que reivindican algunos sindicatos y es que es verdad que quizás algunos sindicatos son un poco inocentes porque la patronal hace lo mismo

mientras algunos sindicatos abiertamente hablan de confrontación la patronal siempre es más sutil y utiliza otro tipo de eufemismo por eso voy a volver a repetir una frase que también

en la que es una de las pocas ocasiones en que algún representante del mundo empresarial y patronal habla con claridad y es aquella célebre cita del inverso warren buffett cuando dice que efectivamente hay guerra de clases pero primero es mi clase la clase de los ricos la que la están haciendo y segundo es mi clase

pocas veces se habla con esa sinceridad y cuando en el panorama de las relaciones laborales de este país

alto nivel de confrontación y de enfrentamiento entre las partes

a un capricho sindical ni a una decisión de crear confrontación porque sí ni de hacer huelgas porque sí sino responde a una respuesta

sistemática de la patronal de recortar derechos y de recortar salarios a los trabajadores y trabajadoras

por gobiernos tanto en madrid como en gasteiz la reforma laboral que hizo el gobierno del partido popular que daba continuidad a otras reformas anteriores tiene como objetivo expreso la destrucción de las relaciones laborales la desprotección de la clase trabajadora

para defenderse mediante la negociación colectiva eso tiene como objetivo expreso lograr los objetivos y como resultado obtener lo que llaman eufemísticamente devaluación interna es decir bajar los salarios y eso no es casualidad eso se busca y la patronal vasca está aplicando esa legislación de forma consciente precisamente para lograr ese objetivo

es una decisión impuesta por la patronal y yo creo que es mejor que haya confrontación a que haya sumisión cuando vienen a recortarte derechos y a recortarte salarios no es un apriorismo la paz social es una consecuencia de unas relaciones laborales y sociales justas

es una respuesta legítima y necesaria ante el ataque generalizado que están sufriendo sus derechos esan daiteke azken

y como fuerza de izquierda que somos seríamos absolutamente irresponsables si no tuviéramos en cuenta esas críticas afortunadamente a pesar de que nosotros compartimos buena parte de esas críticas esas objeciones se refieren más a las carencias del acuerdo que a las presencias es decir critican por insuficiente y porque faltan cosas más que criticar lo que realmente se ha firmado que consideran más o menos satisfactorio aunque insuficiente

este acuerdo y para seguir desarrollándolo y añadiendo cosas que puedan faltar y es verdad que este acuerdo llega en un mal momento llega en un mal momento en referencia a las relaciones laborales

un acuerdo de empleo que ha dinamitado la mesa de diálogo social mesa de diálogo social en la que ya faltaban los dos principales sindicatos es decir no tenemos una buena situación en el mundo laboral

en el compromiso de este gobierno para alinearse con la mayoría trabajadora de este país y sus derechos más bien vemos exactamente todo lo contrario un alineamiento clarísimo con la patronal que está dictando la política económica que está dictando la política fiscal que está dictando la política presupuestaria la política industrial y también la política de empleo evidentemente hoy llegamos a un acuerdo de consenso entre otras muchas cosas por las buenas artes de la asociación

pero tenemos también que manifestar que a partir de ahora será muy dificultoso llegar a acuerdos

que sustentan a este gobierno porque entendemos que su actitud de sumisión absoluta a la patronal hace muy difícil que nos encontremos eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna

eredu bat euskaditik desde que firmamos esta proposición no de ley

distintos comentarios destacaría uno que se ha repetido varias veces me preguntaban si nos proponíamos cooperativizar toda la economía vasca

no simplemente respetando la libertad de elección de cada cual a la hora de conformar su empresa ponemos a disposición un modelo

que consideramos socialmente más justo y absolutamente enraizado al país con la necesidad que hay de ello en los tiempos que corren un modelo que pueda contribuir

a esas preguntas que se nos inquirían de dónde saldrán los empleos del futuro cómo serán esos empleos

bere egunerokotasunean eta eskolak eta haurreskolak ezarritako ordutegiak jarraitzea justamente un artículo publicado el mes de septiembre del año pasado

de que el periodo de adaptación escolar condicionaba y yo creo que esa es la palabra condicionaba

aunque este año las matriculaciones hayan descendido no hay duda que es un problema que tiene

el y la que puede no el que quiere uno de los artículos publicados estos días en relación a este tema recogía testimonios de padres y madres

una decía que apañarse no es conciliar y efectivamente apañarse no es conciliar

mi conciliación son mis padres mi tía y mi familia

en este sentido también hay un dato muy significativo un dato que proporcionaba un estudio del gobierno vasco y decía que

una de cada cinco abuelos y abuelas más abuelas que abuelos cuida casi

cinco horas que aunque no lo consideren una carga son muchas horas

de la vida laboral y familiar que afectan principalmente a las parejas jóvenes

se menciona también que hay un crecimiento ligero en los últimos años en el porcentaje de población ocupada que señala un alto grado de dificultad para conciliar el trabajo con el cuidado de los hijos e hijas menores de edad también ha crecido en los últimos años

o calendario laboral a las necesidades de cuidado el propio plan reconoce además

laboral y familiar muy mejorable un sistema que es muy poco favorecedor de la igualdad entre hombres y mujeres

que tiene un sesgo económico importante y

que se convierten en una especie de trampa

de las mismas la cuestión es que en esa reformulación en esa necesidad que tenemos de diseñar políticas de conciliación entre la vida familiar

en todo lo que es la vida que sean verdaderamente efectivas al hablar de la conciliación de la vida familiar y laboral es verdad que nos encontramos con diferentes intentos

hemos visto también estos días en la prensa ejemplos de empresas que han dado pasos en este sentido hemos visto también experiencias como el de los turnos anti estrés

esta cuestión nos parece fundamental pero en todo esto hay una pata que falta y es la pata que supone la vida familiar

lo que es la escuela y los horarios escolares desde nuestro punto de vista no se puede abordar el tema de la conciliación familiar y la vida laboral sin incorporar el elemento de la escuela y sus horarios en esa ecuación

no vemos que se estén dando pasos ni siquiera es un tema que se mencione en el plan de apoyo a las familias bizitza lana eta hezkuntza munduaren arteko haustura horiek zuzentzeko

desde nuestra coalición desde luego compartíamos y compartimos

la justificación de la iniciativa y la explicación que ha dado la señora

en nuestra sociedad compartíamos el punto de vista de trabajar en un

entre el mundo del trabajo entre las jornadas laborales y los horarios escolares aunque sí nosotros

en los horarios y en las jornadas de trabajo porque pensamos que los horarios escolares la prioridad a la hora de establecer los horarios escolares

del alumnado en general nosotros pensamos que

trata de paliar una contradicción que vivimos en nuestro modelo que es una contradicción capital vida en este caso en lo que respecta al cuidado

y por lo tanto compartimos la justificación y el objetivo de la iniciativa y además nos parece oportuno que en la iniciativa

dos acciones concretas en el sentido de estudiar cómo podemos

abordar esa contradicción entre capital y vida en el caso de los cuidados de los menores y además proponía en este caso eh bildu que se hiciera un

quebradero de cabeza para el gobierno a la hora de ponerlo en marcha no sé si tal vez es lo que ha llevado a los grupos que sustentan al gobierno

a no llegar a un acuerdo pero a nosotros nos parecía pues realmente interesante y luego nosotros hacíamos una aportación que ha mencionado

y que explicaré pero antes de explicar sí que queríamos dar nuestro punto de vista porque pensamos que este problema y esta contradicción que sufren cientos de miles de familias y de mujeres

es producto del sistema socio económico en el que vivimos es producto del sistema capitalista en el que vivimos en el que en el centro del esquema

y en la periferia están las necesidades de vida de la gente y de la gente trabajadora y en este caso las necesidades que tiene que ver

en la esquina de ese esquema están los derechos de los menores en contraposición con las necesidades

y también en el centro del esquema están las tareas productivas del sistema y en la esquina las tareas reproductivas

el cuidado de menores precisamente tareas reproductivas que como sabemos son invisibilizadas se relegan al ámbito privado

y recaen siguen recayendo en las mujeres y esto nos parece muy importante como marco para entender también

a la hora de abordar esta cuestión nosotros pensamos que a la hora de abordarla hay dos elementos sobre los que hay que incidir uno

el tema de los horarios y jornadas laborales saben ustedes que es una cuestión que nos preocupa a nuestro grupo y sobre la que ya hemos registrado más de una iniciativa en este parlamento pero también sabemos qué modelo tenemos las dificultades que hay

que hay pero pensamos que por ahí es donde hay que abordar el tema de los horarios y el segundo elemento es la corresponsabilidad de las tareas reproductivas y en concreto de las tareas de cuidados de menores corresponsabilidad entre géneros entre mujeres

pero también corresponsabilidad colectiva del conjunto de la sociedad y el punto primero de la enmienda de partido nacionalista vasco y partido socialista apuntaba en cierto modo a esta

corresponsabilidad social pero no concretaba nada más que es lo que nosotros hemos querido hacer con el punto que hemos introducido porque luego

no tienen nada que ver con que los abuelos se encarguen de los cuidados de los menores cuando los padres no pueden y nosotros por eso hemos añadido un punto a la iniciativa que tiene que ver concretamente con esa corresponsabilidad social que para nosotros

a través de las administraciones públicas y a través de los recursos públicos a través de lo que es y de todos a través de las administraciones que como administraciones que como instituciones nos hagamos responsables de

los menores en la medida en que sabemos que madres y padres no pueden atender a los cuidados de los menores todo el tiempo que los menores necesitan esas

ese punto para que se estudie sí pero para que se estudie con unos objetivos concretos que es el de dotar desde la administración pública los medios necesarios

en los periodos que se han mencionado porque es verdad que no puede ser que cuando llega el verano las madres y los padres se vuelvan locos con a ver qué hacemos con las niñas

y porque no se trata solo de meterles en algún sitio durante el tiempo que no pueden estar con los padres se trata de que haya o es lo que nosotros pensamos que debería haber

potente que se encargue de cuidados de menores cuando madres y padres no pueden atender

esas tareas es lo que nosotros proponíamos en la iniciativa que está incluido y por lo tanto pues nosotros votaremos a favor

de la iniciativa pensamos que es una buena iniciativa que es humilde que es perfectamente realizable y pensamos también que podía haber contado con el respaldo de todos los grupos a nosotros esto

explicar en primer lugar por qué nuestro grupo va a apoyar este tipo de iniciativas bien si ustedes recordarán en el pleno de política general

el señor alonso dejó bien claro que probablemente el problema más urgente que tiene euskadi es el demográfico es el demográfico es decir y todo lo que hagamos en esta línea nuestro partido lo va a apoyar les voy a dar algunos datos les voy a dar algunos datos

no creo que llegue a una semana en euskadi en el año pasado nacieron

niñas y niños y eso supone mil ciento ochenta y cinco bebes menos que el año anterior

un seis coma cinco menos que el año anterior

por ciento ustedes imaginen si no rompemos esta dinámica

de suicidio demográfico como se dice es un problema de que en quince años nos extinguimos los bebes se extinguen en euskadi si no rompemos

esta dinámica porque multipliquen seis coma cinco por quince ya tenemos el cien por cien acabo niños no hay

el ochenta por ciento de las madres superaban los treinta años la media en las extranjeras era de treinta coma seis y en las españolas treinta y cuatro coma cuatro

que para paliar muchas veces la falta de conciliación se ha echado mano de abuelos y abuelas vamos a ver si una persona tiene

treinta y cuatro coma cuatro años supongamos que este modelo se reproduce pues resulta que el abuelo y la abuela tienen sesenta y nueve

y si van a tener varios nietos que les suponga cuidarlos digamos durante doce años porque van naciendo cada dos años cada tres años van naciendo

tenemos abuelos cuidando de nietos a los ochenta y pico años y esta es la realidad también se rompe el modelo

porque al aumentar en la edad del primer hijo lógicamente aumenta la edad de los abuelos y es que estoy

con ochenta y dos años que están cuidando a nietos

y el de reposición es el dos coma uno pero cuándo perdimos el índice de fertilidad que posibilitara la reposición es que lo perdimos en mil novecientos setenta y nueve francia por ejemplo que es un país que tenemos al lado está en el uno coma noventa y dos pero cuándo perdió la tasa de reposición en dos mil trece cuando vino ya se notaban los efectos vamos estaba la crisis en su apogeo hasta dos mil trece reponía su población nosotros desde mil novecientos setenta y nueve no reponemos nuestra población y se me dirá bueno y una de las cosas que hemos oído y

en toda españa que vengan a trabajar entre nosotros nosotros siempre pensamos en contratos y una inmigración ordenada y se tasa para toda españa en cuatrocientos mil personas nosotros no sabemos si son

pero sí que tenemos el ejemplo de francia que lo ha estudiado lo ha estudiado porque ellos llevan teniendo procesos inmigratorios pues prácticamente desde el fin de la colonización la primera gran ola

no sé si es un término despectivo y sí es así lo siento pero es como

han descubierto que la segunda generación de inmigrantes imita el modelo de los autóctonos

que ese mayor capacidad reproductiva de esa población se elimina en dos generaciones o sea que tampoco es el bálsamo de fierabrás y por qué se eliminan dos generaciones pues por muy claro nos lo dicen los antropólogos una comunidad

por dos motivos primero porque esa comunidad ya tiene un sistema para cuidar de los mayores que no hace que se tengan hijos

cosa que afortunadamente pasa entre nosotros y cuando baja el índice de mortalidad infantil es que estamos hablando que a finales del diecinueve todavía

dos individuos que se reproducían en el momento que eso baja eso lo dicen los antropólogos no es un problema

atención de los mayores más o menos cubierta y descenso de la mortalidad infantil suponen inmediatamente una bajada de la fertilidad

a vivir entre nosotros desde luego nos enriquece siempre y cuando sea una inmigración ordenada y nos enriquece

pregunten a los franceses la segunda generación copia los modelos reproductivos de los autóctonos por todo esto

el cuarenta y cuatro por ciento de los niños nacidos en euskadi este año pasado es de madres no casadas eso no quiere decir que sean madres que no tengan pareja desde luego en algún momento han tenido pareja porque si no no se entendería que

hay muchas parejas que no quieren regularizar su situación y eso es aceptable pero también puede haber en este grupo muchas familias que están destinadas a ser monoparentales no sé a ustedes les hace mucha gracia pero

no nazcan en un marco jurídico estable que proteja sus derechos porque el matrimonio fundamentalmente

ofrece un marco jurídico estable para los menores

pero a nivel de herencias a nivel de cuidados a nivel de la obligación de contribuir

y a la educación de ese menor el marco jurídico estable que es el matrimonio es el que mejor lo garantiza y el cuarenta y cuatro por ciento de las

el año pasado no cuentan con ese marco jurídico estable para proteger a sus criaturas para obligar a los padres

que den la cara a mí eso me preocupa entonces en mi siguiente intervención estaré encantada de mostrarles algunos ejemplos de cómo funcionan otros países que consiguen tener su tasa de más elevada pero ahora solo les quiero repetir que para nosotros este es un problema fundamental en euskadi uno de los primeros

tiende a conseguir que solucionemos en parte ese problema nosotros siempre vamos a estar de

proposición no de ley presentada por el grupo eh bildu referente a la realización de un estudio para llevar a cabo el proceso de armonización del horario

la vida laboral con ese horario escolar hablamos de la necesidad de avanzar en la sincronización de dichos horarios así como avanzar en el reparto equitativo de las labores domésticas y educativas de nuestros hijos e hijas

las mujeres deben ser compartidas entre todos los miembros en eso estamos todos de acuerdo solo que la realidad todavía

pues está lejos de que se comparta al cien por ciento

y avanzar en ellas es avanzar en igualdad porque son las mujeres las que más sufren las consecuencias de esa falta de armonización y obliga a que

en septiembre al inicio del curso escolar tengan que

esos horarios y tengan que recurrir a diferentes posibilidades como pueden ser los abuelos como se ha dicho o

de ocio alternativos y recientemente hemos debatido dentro de

de política familiar y el desafío demográfico que se debatió en el pleno del veintiuno de marzo y se ha presentado también recientemente dentro de la comisión de

el trece de septiembre pasado y siendo su realización un compromiso prioritario para los socialistas firmados dentro del acuerdo

de la legislatura estamos dando pasos adelante

apoyo a las familias se pone de manifiesto que no hemos conseguido revertir la tasa de natalidad ni la perpetuación de la desigualdad que

se quedan en casa al cuidado de los menores y de los mayores que se les expulsa de sus carreras profesionales que tienen muchas más dificultades por ello

parciales incluso también a tener más riesgo de pobreza cuando se jubilan todos somos libres a la hora de elegir la familia que consideremos más adecuada pero si apostamos

la conciliación de la vida laboral y el cuidado de esos hijos e hijas nosotros hoy defendemos nuestra enmienda

y nosotros no porque no estemos de acuerdo evidentemente en dar pasos adelante en la conciliación he puesto de manifiesto que aquí acabamos de debatir hace poco en un monográfico tenemos el cuarto plan de apoyo a las familias recientemente

dentro de la comisión correspondiente pero creo que es dentro de esos planes que existen ya creemos que dentro de esos planes se pueden realizar esos estudios

junto con otras materias incluso creo que lo más importante es avanzar en la sensibilización y en esa sensibilización a la necesidad de realizar y de avanzar en la

para que dentro de las empresas se cambie y se pueda facilitar a los trabajadores esa armonización

nada dice no hace ninguna referencia a la necesidad de esas campañas de sensibilización

y hacer hincapié en ese tema que para nosotros es fundamental de nada sirve realizar magníficos estudios si no conseguimos que dentro de las propias empresas que es donde radica el principal problema a la hora de poder armonizar fundamentalmente las empresas privadas porque en el ámbito de la administración pública obviamente es más fácil dar más pasos en este sentido pueden

de las administraciones para hacerlo pero en el ámbito privado es muchísimo más difícil y tiene que entrar ese cambio de cultura

armonización porque podemos tener estudios maravillosos que los podremos tener metidos en un cajón pero no nos servirán para nada mientras ese cambio de cultura

que hoy se va a aprobar firmada por el grupo eh bildu el grupo proponente y el grupo de elkarrekin podemos no hace referencia en ningún momento a esas necesidades y sensibilización que para nosotros muy importante esa es la única razón por la que nosotros hemos considerado que no íbamos a firmar esta iniciativa pero ya voy a adelantar que sin embargo nos abstendremos porque evidentemente

el ámbito de la conciliación pero

que se tienen que llevar a cabo además y que está recogido así dentro

plan interinstitucional de apoyo a las familias dos mil dieciocho dos mil veintidós

y además dentro de su eje segundo hace referencia una serie de medidas también para llevar a cabo

introducir medidas que faciliten la conciliación de la vida personal familiar y laboral para las personas que trabajan dentro del sector público

y familiar en los convenios colectivos importantísimo a la hora de avanzar para poder facilitar a los trabajadores como he dicho antes esa armonización impulsar proyecto pilotos y planes de conciliación de la vida personal familiar y laboral en las empresas

es lo que está poniendo fundamentalmente las mayores dificultades y las mayores trabas en esa armonización por tanto nosotros como he dicho evidentemente defendemos nuestra enmienda a la totalidad porque recogía esa necesidad de sensibilización que para nosotros es muy importante pero evidentemente como he señalado nos vamos a abstener y no

porque consideramos que cualquier avance que se haga en el ámbito de la conciliación desde luego para nosotros

pero creo que no servirán de nada todos esos estudios

si no avanzamos en esa sensibilización que tienen que tener las empresas que es donde está la gran mayoría de las mujeres y

y de todos los ciudadanos que tienen que conciliar cuando tienen esos hijas y esas hijas si no se les facilita desde esa vía esa armonización porque no serviría

su preocupación ante la situación de conciliación que se nos plantea a muchas familias con hijos e hijas pequeños ante la disparidad de horarios laborales y escolares

son somos plenamente conscientes de la problemática que supone para las familias en las que los dos adultos trabajan fuera de casa la conciliación familiar en los periodos vacacionales qué hacemos con los niños qué actividades colonias hay cerca y qué horarios tienen cuánto cuestan cómo tienes esta semana llamas a tus padres para tal día que los míos no pueden conversaciones muy habituales en familias con menores cuando se acercan los periodos vacaciones onartzen dugu

lan mordoa egiteko entendemos que la iniciativa tiene mucho buenismo pero poca practicidad antes de llegar a la armonización de los horarios

trabajo de pedagogía romper los tabús los miedos al cambio si queremos parecernos a los países avanzados de europa deberíamos acostarnos

comenzar antes nuestras jornadas laborales comer picar algo rápido no programar de forma habitual reuniones al final de la jornada y salir del trabajo a una hora tener

cumplirla cumplirla también requieren un esfuerzo de todos y cada uno de nosotros eta honen inguruan politikariok

ez dut esan nahi beste batzuk baino txarrago gaudenik inolaz ere ez no tenemos horario establecido para lo bueno y para lo malo el otro día

las medidas que habían implementado en su empresa para favorecer la conciliación medidas como flexibilidad horaria de entrada y salida flexibilidad para coger vacaciones

porque los cambios cuestan dijo valoraba las medidas como muy positivas

que está más contenta con su trabajo en general experiencias como el teletrabajo son también pasos adelante que ayudan a la conciliación

y ni tan siquiera son del todo bien vistas por sectores amplios de nuestra sociedad planteatutako gaiak garrantzi itzela du dudarik gabe

una armonización del horario laboral y escolar nos parece fundamental que se lleve a cabo como una medida

entendidas como un todo que favorecen la conciliación

eztabaidara eta hori uste dut zilegi dela eta ez dela inolako arazorik a la señora sánchez le diría que el planteamiento que usted dice de la sensibilización es perfectamente compatible con lo que se plantea en esta iniciativa

pues probablemente la hubiéramos incluido porque efectivamente hay que hacer ese trabajo con las empresas efectivamente hay mucho que abordar hay cuestiones que se abordan también en el plan

que esa armonización para que podamos tener tiempos para la vida se pueda dar

me parecen muy interesantes y no considero que sea excluyentes

sí a nuestro grupo la verdad que esta iniciativa en caso

luego en qué marco se lleve a la práctica

si pnv y eh bildu han discutido de esta cuestión pero no creo que ese sea el inconveniente para haber llegado a un acuerdo

supongo que si alguien se lo hubiera propuesto al grupo proponente pues estaría ahí porque mi grupo desde luego tampoco tiene nada en contra de incluir el tema de la

ahora sí yo sí voy a decir una cosa cada vez que tenemos debate de este tipo sobre estas cuestiones o cuestiones que atañen al mundo del trabajo y al mundo de las empresas hacemos mucho hincapié al tema de la sensibilización yo

pienso que el principal foco no es ese yo creo que si a estas alturas quienes gestionan y dirigen las empresas y esta mañana hemos tenido un debate sobre modelos de empresas

no vamos a sensibilizarles tal vez podamos convencerles con argumentos porque les convenga cambiar de modus operandi pero la cuestión no está en sensibilizarles y por lo tanto yo creo que la iniciativa podía haber sido perfectamente aprobada por todos los grupos y no sé exactamente

demasiado el resto el foco está precisamente en la cuestión de armonizar

de los cuidados y por lo tanto en el mundo del trabajo en el mundo de la empresa y también en el mundo de lo público en el mundo de la administración y por eso nosotros añadíamos el punto tres que es una propuesta muy concreta

porque podré dar nuestra opinión no señora arregi

y nosotros lo que proponíamos es una cosa muy concreta que es todo lo contrario a una propuesta buenista

que estudiemos el tener un sistema público para abordar esa cuestión de cuidados porque usted preguntaba qué pasa con quienes trabajan de noche y tiene razón señora arregi nunca vamos a poder modificar los horarios laborales

por eso nosotros proponemos que haya un sistema público que pueda encargarse de esas cosas y por lo tanto no es una iniciativa

hablando de auzolana y luego firmar acuerdos con la patronal si siquiera hablar con los sindicatos eso sí que es buenismo

y que queda muy feo votar en contra de esta iniciativa en cualquier caso a nosotros nos parece una buena iniciativa nos parece que propone cosas concretas

en qué marco la vaya a desarrollar el gobierno pero lo que sí nos parece importante es que el gobierno se comprometa a llevar a la práctica una pnl que se aprueba hoy que es algo que no siempre pasa eskerrik asko

señora arregi cómo vamos a haber cambiado de opinión se lo repito cuando

estableció que en su opinión y en opinión del grupo este es uno de los mayores retos que tenemos y nosotros no hemos hecho seguidismo que tampoco tengo que porque disculparme pero vamos es que se lo quiero explicar porque creí que usted ya lo sabía

hemos hecho una transaccional en la cual figuran nuestras aportaciones y entonces por qué no en un tema que es tan importante para el país vasco y mire tiene toda la razón cuando usted decía que los que trabajaban a txandas a turnos

a esta armonización perfecta de horarios bueno sanitarios policías

gente que trabaja en la construcción pero que llueve durante un tiempo y no pueden trabajar y entonces tienen que meter muchas horas cuando hay muchas razones y aunque no es pertinente exactamente

déjeme que le ponga unos ejemplos de que se hace por ejemplo en francia para facilitar la conciliación de la vida

del segundo hijo el primer hijo a no ser que la familia gane

no tiene una protección extraordinaria pero vamos a ver a partir del segundo hijo y hasta unos ingresos de setenta y cinco mil uno euros las familias reciben

hasta los tres años y a partir del tercer hijo doscientos noventa y nueve

que es un complemento familiar hasta que los hijos cumplen los veintiuno años

hay una deducción del cincuenta por ciento en los gastos de contratar a una persona

no digo cincuenta por ciento en la declaración fiscal sino que digo cincuenta por ciento de lo que cuesta esa persona incluida la seguridad social y eso es así hasta que el niño tiene seis años

paga ochenta céntimos por hora en una guardería es decir unos cien euros por los tres si son dos solamente ciento diez euros ochenta céntimos los ingresos tope para este

y le voy a poner un caso concreto que es una amiga mía que vive en francia y tiene tres niños

están muy bien pero en francia es un poco menos vamos a ver el tercer hijo

que ha costado veinticinco euros al mes por cinco horas diarias y además como han tenido que contratar a una persona durante cinco horas en casa

la comida en el colegio la comida en el colegio cuesta desde diez céntimos hasta cuatro euros dependiendo de los ingresos familiares esta amiga mía con tres hijos y tres mil novecientos euros de ingresos paga ochenta céntimos

veinte menús al mes le salen dieciséis euros por niño

la comida se termina de cocinar en el centro solo traen algunas cosas pre con lo cual eso que décimos los

actividades extraescolares gratuitas tienen dos días a la semana estas actividades extraescolares gratuitas y pueden elegir entre

flamenco danza moderna inglés alemán castellano rugby golf

pintura teatro jardinería y no leo lo que he puesto ahí algo más

hasta los catorce años no pagan por supuesto libros y hasta los cuadernos se les entregan en el colegio la entrada en el colegio a las familias les cuesta veinte euros que es un estuche y tres bolígrafos y según los ingresos de la familia pero a esta amiga mía le corresponde y tienen tres mil novecientos euros de ingresos al mes que en francia es menos que aquí

reciben trescientos euros cada niño para ropa y calzado a ver yo no sé si esto que les he descrito es mucho poco sí lo podríamos afrontar estoy casi segura de que no pero

no solamente los horarios también es todo esto y sabe porque se lo he dicho porque mire ustedes tienen esta cosa que les encanta compararse con otros países porque euskadi respecto de francia

tienen una media entre las regiones más desarrolladas y la regiones más pobres

con las regiones más desarrolladas de esos países porque claro italia da una media porque tiene un norte muy rico

una región muy desarrollada y quedamos guay del paraguay bueno

esto es lo que hacen en esos países con los que nosotros nos comparamos muchas gracias

yo lo que voy a hacer es relatar un poco lo que ha pasado también en el proceso de negociación

de esta iniciativa hoy evidentemente el grupo popular se acercó al grupo nacionalista vasco y al grupo socialista porque quería llegar a una enmienda transaccional

se la propusimos la callada por respuesta hasta esta mañana a punto de empezar el pleno esa ha sido la negociación con el partido popular

esperando una contestación evidentemente si se está esperando una contestación no te pones a ampliar por otro lado a lo mejor la enmienda transaccional porque estábamos convencidos de que el partido popular es lo que había hecho aquí ha llegado diciendo nosotros os apoyamos cualquier medida de conciliación

y lo que ha hecho es no decir ni pio hasta que entrabamos en el pleno eso es lo que ha hecho el partido popular

desde el grupo nacionalista vasco al grupo socialista porque no ha hecho ni la más mínima intención de cambiarla negociando una enmienda transaccional y no le gusta intente cambiarla

es que he pensado antes de entrar al pleno que voy a apoyar la enmienda transaccional en su derecho están

para acercarse absolutamente para nada entonces eso ha sido un poco lo que ha pasado con esta negociación de esta enmienda de lo de hoy en el grupo eh bildu y el grupo podemos no le digo nada porque no he tenido nada que ver señora kortajarena no se me revuelva porque ya que no han tenido nada que ver con esa negociación pero claro luego llega aquí como muy bueno el partido popular y dice no no es que siempre vamos a estar apoyando cualquier cosa que mejore la conciliación no lo han intentado con nosotros dijeron que tenían esa intención y a partir de ahí han hecho y hasta hoy porque no han propuesto nada si no estaban de acuerdo con lo que se les proponía

pues claro eso es lo que ha impedido también un poco un juego a lo mejor también un poco más amplio no pasa nada

el gobierno yo creo que está perfectamente concienciado en esa sensibilización cuando yo he hablado de la necesidad de hacer campañas de sensibilización evidentemente no estoy hablando del gobierno que ya está sensibilizado no necesita sensibilizarse con una campaña el gobierno

sensibilización van dirigidas a que los que tienen que aplicarlo en el ámbito empresarial

de cultura falta todavía mucho ahí porque ahí no se facilitan en muchos casos y se ponen muchas trabas a los trabajadores a la hora de conciliar no se meten medidas o se meten muy escasas medidas dentro de los convenios colectivos en el tema de conciliación etcétera etcétera

mucho camino por recorrer y que es bastante importante a la hora de armonizar porque ahí es donde van a tener luego

homogeneización o armonización entre el horario laboral y el horario escolar

también en mi intervención en eso yo creo que estamos absolutamente todo el mundo de acuerdo porque cuantas más facilidades se den a las familias desde luego más facilidades se pondrán para conseguir ese incremento de la natalidad que también es importante conseguir a futuro dentro de nuestra propia sociedad y que es una de las políticas que se intentan conseguir también dentro del cuarto plan de familia y la infancia desde luego desde el respeto

es importante para una sociedad adoptar medidas en ese sentido eso es lo que he dicho y entonces pues por eso nosotros hemos

y no vamos a defender nuestra enmienda a la totalidad porque consideramos que avanzar en conciliación todo lo que sea avanzar en medidas que se puedan adoptar en conciliación
es bueno por eso simplemente nos vamos a abstener nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea eta amaitzeko euzko abertzaleak arregi andrea zurea da hitza

como bienintencionado o sea creo que

eta horregatik abstenituko garela ez gaudelako kontra guk uste genuen nosotros creíamos señor hernández que tenía encaje en ese paraguas y en ese plan
en las medidas que se habían aprobado en este mesedez

informes que ya se van a hacer y también esos planes pilotos que están contemplados

cómo habían ido las negociaciones y no voy a volver a insistir en eso

incluir de los servicios públicos le tengo que decir que hay medidas concretas no una sino varias ya recogidas en el plan en el tema del ocio que además en muchas de las ocasiones son competencia municipal pero cuando se habló en el plan monográfico sobre esto se contemplan específicamente y fueron aprobadas por unanimidad ya están en el plan me parece bien que se recoja aquí o sea

no hace daño pero ya están contempladas y no en una sino en varias ocasiones porque fue un tema bastante recurrente

en el plan monográfico y se ha recogido en medidas concretas respecto al partido popular

la demografía es uno de los mayores retos y también lo compartimos lo dijo el señor alonso

las negociaciones del pnv con eh bildu y cuando se le dijo que ustedes también llegaban a acuerdos el señor alonso dijo que coincidían que no pactaban y hoy casualidad

que por supuesto que es legítimo pero que no vale decir una cosa y después poner en la práctica otra bien distinta respecto a lo que me decía de francia y el ejemplo concreto que nos ha dado de su amiga no tengo los datos por supuesto

y es cierto que francia es uno de los países que se han mirado a la hora de hacer el plan la incidencia que usted decía y la importancia de las ayudas a partir del segundo hijo países a los que se ha mirado a la hora de poder desarrollar este plan y es cierto también que usted no ha mencionado que en francia se llevan tomando estas medidas desde hace muchos años y que la problemática para solucionar

problema que tenemos importante problema demográfico en este país las medidas que vayamos tomando no van a tener consecuencias a corto plazo no son de hoy para mañana

vayamos entre todos acordando diferentes iniciativas porque creo que en el fondo todos

avanzando y creo que la pedagogía es muy importante y que todos los sectores y que es un tema muy transversal debiéramos de remar en la misma dirección para conseguir

de la que puede formar parte también la armonización de los horarios escolar y laboral besterik ez mila esker eskerrik asko